existen numerosas razones para el encuentro y la colaboración entre la comunidad foral de navarra

en muchos campos campos diversos como el de la cultura e i te be las infraestructuras viarias y ferroviarias los órganos transfronterizos de cooperación el concierto y el convenio económico las policías propias por citar solo algunas de ellas

ambas comunidades habíamos vivido prácticamente de espaldas por la falta de voluntad de colaboración

de los anteriores gobiernos de navarra pero a juzgar por las informaciones sobre el resultado de la reunión del viernes pasado

parece que afortunadamente se inaugura un nuevo tiempo en las relaciones mutuas

un nuevo tiempo que saludamos desde nuestro grupo que nos alegra y al que ofrecemos nuestra total colaboración y apoyo horregatik guztiagatik

la valoración de la reunión con la presidenta de navarra uxue barkos es positiva

muy productiva supone normalizar relaciones entre dos comunidades que compartimos historia cultura y realidad social como usted bien ha dicho señor iturrate partimos de una realidad sostenida en el tiempo lo demuestran protocolos de colaboración y convenios firmados entre el gobierno vasco y gobierno de navarra algunos

desde mil novecientos noventa y dos así como también acuerdos adoptados con respaldo parlamentario hoy sin efecto el espíritu es de superación queremos avanzar y extender esta relación aspiramos a crecer en autogobierno queremos colaborar en el marco del arco atlántico

en europa esta primera reunión ha centrado la agenda de trabajo en seis ámbitos infraestructuras de comunicación con la conexión ferroviaria como prioridad mejora de los servicios públicos como educación o sanidad próximamente se ratificará el convenio de asistencia sanitaria reactivación económica queremos compartir proyectos en internacionalización turismo

cultura y euskera coparticipamos en euskaltzaindia y vamos a trabajar para facilitar la recepción de etb en nafarroa seguridad

de prevención y de formación y defensa del autogobierno y la capacidad fiscal propia del convenio y el concierto económico vamos a trabajar juntos desde el principio de respeto mutuo que ambas partes hemos querido subrayar la disposición es plena y vamos a mantener por lo tanto más encuentros de carácter técnico y también entre la presidenta

fue un encuentro positivo y productivo y yo añado esperanzador eskerrik asko eskerrik asko

en la unión desde el reconocimiento mutuo ejemplo reino unido

lo que haya dicho le pido y le ruego encarecidamente que lo utilice en sus justos términos porque yo en este mismo debate

hablé de la unión voluntaria desde la libre adhesión

además de haber ratificado lo que ha sido el principio de compromiso con el derecho de autodeterminación que el partido nacionalista vasco todavía hace cuatro años ha expresado y no sé si ustedes el principio de derecho de autodeterminación lo defienden tan siquiera en todo caso

participa en la ponencia de autogobierno y yo le digo que entonces o la otra porque si realmente tenemos aquí un problema no se entiende que pretenda las dos al mismo tiempo y en todo caso a mi me parece que este juego suyo no es nuevo

usted declaró unilateral y enfáticamente nos vamos

yo lo que le sugiero es que en lugar de dedicar el tiempo a alejarse más y más de entre todos trate de acercar posiciones con el resto de grupos beraz zuk

lehendakari con el pleno de política general

y es desde luego un debate de gran simbolismo que yo seguí con atención y tengo que reconocer que escuché con agrado cuando refiriéndose al eventual recurso del gobierno central de la ley de vivienda

contra las decisiones de este parlamento que toma las políticas necesarias y por lo tanto debo de reconocer que me causó satisfacción que usted afirmara que

que usted defendiera nuestras competencias porque es lo que lógicamente se espera de un lehendakari sin embargo y recientemente en el boletín oficial del estado ya ha aparecido el acuerdo de la comisión bilateral para llevar adelante los trabajos que resuelvan las discrepancias

en defensa de nuestras competencias qué argumentos maneja o va a manejar el gobierno eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor itxaso los argumentos que defenderá el gobierno vasco serán criterios de legalidad y le cito algunos de ellos uno

que pueda suponer la actuación que se determine contraria a la función social del derecho de propiedad que no constituye a nuestro modo de ver una definición del contenido esencial de dicho derecho por tanto

a las condiciones básicas de la igualdad asociadas al título competencial del artículo ciento cuarenta y nueve de la constitución ni constituye legislación civil competencia exclusiva del estado segundo argumento que utilizaremos es el de que cualquier definición del concepto de vivienda deshabitada no tiene por qué ser reputada inconstitucional como afirma la sentencia noventa y tres barra dos mil quince del tribunal constitucional tercer argumento que utilizaremos es que la figura de la expropiación forzosa temporal

hipotecaria no afectan al uso por el estado de su título competencial de ordenación general de la economía

que no es de aplicación el derecho procesal y el título competencial estatal asociado al mismo

no se vulnera el principio de unidad de mercado en relación con la regulación del ejercicio de su actividad económica por los agentes inmobiliarios esto se desprende del acuerdo bilateral

con la ley de garantía de la unidad de mercado estos son los criterios jurídicos que vamos a defender ante la comisión bilateral argumentos de defensa de las competencias vascas

de volver a expresar mi satisfacción porque entiendo que el gobierno ha captado perfectamente el espíritu de la ley y las diferencias

que sí especificaba efectivamente que entraba a definir el contenido esencial de la propiedad no así nuestra ley la ley vasca que habla de la función social la función social de la propiedad viene además establecida en la constitución española

y por lo tanto apreciamos y estimamos que se vaya a defender con vehemencia el hecho de que la propiedad y su función social en el ámbito que nos corresponde se decide

como lo de la vivienda deshabitada efectivamente nos parece también un atropello por parte del gobierno del estado hablar

también plantea la posibilidad eventual de imponer recargos

y por lo tanto sin regular luego después ni desarrollar reglamentariamente qué es una vivienda deshabitada por lo tanto nos corresponde a nosotros en fin

nos complace saber que los elementos importantes y controvertidos de la ley van a ser defendidos en fin como de alguna manera esperaba

la amenaza de un eventual recurso ha planeado sobre esta ley desde el primer minuto desde su toma en consideración

ni a lo que podría devenir de la misma es decir hay ya desde el primer momento con esta ley un afán

nuestro acervo competencial y nuestra capacidad para decidir por lo tanto sabiendo que lo van a hacer en esos términos nosotros le animamos señor lehendakari
a que no ceje en el empeño y ni un paso atrás nada más y gracias eskerrik asko itxaso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

hitzengatik gracias porque ciertamente lo que defendemos es que euskadi tiene pleno derecho a articular sus políticas públicas

las políticas públicas es una injerencia del gobierno de españa que atenta contra el autogobierno vasco y ante lo que usted ha dicho de la amenaza que se ha cernido desde el principio

yo quiero dejar constancia también de que la administración del estado anunció el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda a finales de julio pero que a día de hoy no ha convocado la comisión bilateral de cooperación que debe analizar ese recurso

muchas gracias señora presidenta lehendakari

una presentación el gobierno vasco a través de la secretaría general que dirige el señor jonan fernández hizo público un informe titulado

y este es un informe no es independiente no es imparcial y no es justo una vez más a instancia de parte de la suya la obsesión permanente de este gobierno arremeter contra el gobierno central y otras instancias y ensalzarse a sí mismo los ciudadanos y ciudadanas

esa llamada hoja de ruta del microacuerdo el informe evidencia que el gobierno se siente cómodo en las claves de la distancia política y por eso le preguntamos cuáles son las razones por las que el gobierno vasco utiliza la propaganda y la construcción de la distancia política en su denominada política

no ve señor lehendakari que esto es muy descarado que esto es muy desequilibrado la secretaria de paz y convivencia por su frialdad

o la agencia de protección de datos más que una referencia

por qué señor lehendakari eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio el plan de paz y convivencia fue aprobado en consejo de gobierno el veintiséis de noviembre de dos mil trece

plantea realizar una evaluación externa a mitad de legislatura esta evaluación se contrató mediante procedimiento negociado y se adjudicó

y acción humanitaria mediante procedimiento negociado esta institución acumula una amplia experiencia el instituto de estudios

por citar algunos de los ejemplos de su experiencia diré que elaboró la estrategia de construcción de la paz de la cooperación española al desarrollo

ambos por encargo del ministerio de asuntos exteriores del gobierno español por lo tanto señor barrio usted lo debe conocer el instituto

conformó un equipo de cuatro profesionales expertos

se reunieron con todos los grupos parlamentarios y usted tiene

cuestionar su capacidad y profesionalidad ustedes señor barrio siempre ponen en duda los informes que expertos realizan para el gobierno vasco

con el informe sobre vulneración de derechos humanos y no se podía dudar de la profesionalidad y pluralidad de los autores lo hicieron también

y lo hacen ahora con este informe de evaluación no se puede dudar señor barrio ni poner en duda la honestidad de quien no piensa como nosotros

gracias señor lehendakari procedimiento negociado sí ese negocio siempre le sale mal curiosamente a los mismos y siempre le sale bien al gobierno las obsesiones de siempre señor lehendakari el gobierno central siempre en la picota no ha querido implicarse a fondo renuente falta de voluntad política eso sí también algunos partidos inmovilitas que se aferran a esa situación no van a la ponencia

eso sí la exigencia permanente con la política penitenciaria permanentemente en cada documento que salga lo mismo que sirva para dar al gobierno de españa

que les afecta eso sí llegamos al apartado del gobierno vasco el gobierno vasco ejercicio de responsabilidad política plan

necesario ambicioso adelantado realista equilibrado vivo flexible participativo

esto no es justo señor lehendakari esta es la autocrítica que usted imponía en las claves políticas de las que nos hablaba hace poco esa es la autocrítica pagar informes con dinero público para ensalzar al gobierno y criticarnos a todos los demás yo creo que no es justo

reflexione un poco sobre esta colección de documentos que si las criticamos algunos por algo será no lo hacemos no nos gusta criticar la política del gobierno porque sí

una secretaría que tiene un trabajo tendría que tener un trabajo muy serio esto no es el tribunal de la competencia esto es algo muy distinto que tendría que ser referencia a otras cosas

expertos que aparecen por ahí mediadores verificadores remunerados son la referencia del gobierno vasco para no asumir sus propias carencias señor lehendakari eso es y el propio informe además dice que

a verificadores eso es oportuno también y eso es adecuado eso dice la evaluación también esto no es una evaluación señor lehendakari esto es un conjunto de opiniones esto

paz y convivencia que pagamos todos pero que lo único que hace es ensalzarse a sí mismo ensalzarse usted

usted conoce la pertinencia de los miembros de la comisión del grupo de trabajo

podría decir aquí la procedencia de algunos de ellos podría decirlo para saber si es honesto lo que está acusándoles a dichos miembros sí señor barrio a usted le molesta que cualquier informe critique al gobierno español pero cómo me puede venir usted con esto cuando ustedes mismos como partido popular del país vasco han criticado la falta de diligencia del gobierno español en el final de eta cómo me puede venir usted diciendo

cuando ustedes mismos ustedes mismos han reivindicado del presidente del gobierno español una mayor acción decidida en el final de la violencia el informe señor barrio es una oportunidad para mejorar

opiniones ofrece veinticinco recomendaciones veinticinco recomendaciones y ámbitos de mejora veinticinco recomendaciones y ámbitos de mejora y debemos aprovecharlas

el gobierno vasco lo va a hacer porque también en esos ámbitos de mejora y veinticinco recomendaciones hay también emplazamientos al gobierno subrayo una recomendación que nos invita a salir de ciertas zonas de confort que imposibilitan el acuerdo mire insistir como usted insiste en que el gobierno avala la tesis del conflicto que quiere marginar a las víctimas no me parece a mí que estamos marginando a las víctimas cuando

que pretende igualar o compensar violencias y diluir la responsabilidad de eta además de no ser cierto señor barrio supone generar distancia política nuestra

y espero que ustedes en algún momento se puedan sumar a esos espacios eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua

y a todas señor lehendakari usted empleó en el debate de política general de la pasada semana un término nuevo nación

le diré que en nuestra opinión el término es como los propios derechos históricos o la propia foralidad en fin una antigualla un anacronismo y además es una contradicción en los términos un oxímoron

en fin también es cierto que tampoco importa tanto este malabarismo lingüístico como saber exactamente qué pretende usted al utilizar este término

a dónde pretende llevarnos a todos qué es lo que piensa hacer tengo claro que se trata de una artimaña para avanzar hacia la independencia de momento usted y se lo dije la semana pasada se muestra agazapado y esperando

pero es obvio que el objetivo es ese la independencia antes o después

de su partido político más que darle cancha o llamarle moderado para eso ya están otros yo prefiero tratar de denunciar lo que usted se propone y explicar y repetir que no nos interesa levantar fronteras entre conciudadanos que lo que nos interesa a todos es convivir más y mejor

y desde luego es muy grave romper la convivencia o azuzar el enfrentamiento en fin estamos viendo qué es lo que ha provocado el nacionalismo en cataluña y no queremos que aquí

político euskadi y cataluña caminos diferentes aunque con un mismo ciertamente esto nos preocupa y nos preocupa mucho no nos sorprende porque ya sabemos lo que representa el nacionalismo y en concreto el partido nacionalista vasco pero en todo caso yo quiero

adónde pretende llevar a euskadi qué es lo que pretende hacer usted al reivindicar ese

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro lo que pretende el partido nacionalista vasco me parece que lo va a tener que debatir usted con el señor urizar

en todo caso señor maneiro y saltándome lo que son los adjetivos que usted ha expresado nuevamente

señor maneiro yo le diré que usted participó en el debate y sabe que no utilicé el término nación foral con ningún espíritu reivindicativo

porque fue una afirmación la que yo hice dije lo siguiente y lo mantengo como nación foral que somos nuestros derechos históricos

cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas

reitero lo dicho tanto cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales que sean

que nosotros rechazamos contundentemente como son los derechos históricos

aunque evidentemente puede cambiarse a través de los procedimientos legales establecidos reivindicamos el estado de derecho reivindicamos la ciudadanía democrática la ciudadanía compartida

que mirar hacia el pasado creo que la sociedad tiene que mirar hacia el futuro

que levantar nuevas fronteras entre conciudadanos mire señor lehendakari creo que no vamos a ponernos de acuerdo en el tiempo que queda durante esta es imposible pero mi obligación es confrontar con usted defender mis ideas y criticar las suyas y dar argumentos sobre todas estas cuestiones yo le quiero hacer un regalo hoy

de fernando sabater espero que lo lea con atención porque es una joya y creo que le merecería la pena que pueda leerlo
isiltasuna mesedez no le voy a pedir que haga un resumen para entregármelo dentro de algunos meses pero

lo lea lo lea con atención y seguro que usted aprende de este libro tanto como tantas otras personas han aprendido al leerlo reivindica valores como la ciudadanía la ciudadanía democrática la ciudadanía compartida la solidaridad y la igualdad lo dicho una joya léalo y
dentro de unos meses me comenta qué le parece gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

menos mal señor maneiro que me ha dicho que dentro de unos meses le comente a ver qué es lo que me ha parecido y no me ha dicho que me someterá un examen sobre el libro bien en todo caso no sé si fernando sabater escribió esto en el año dos mil uno

en relación a lo que es la unidad de españa en todo caso

señor maneiro yo humildemente sin libro que regalarle apelo

tiene que tener usted en el frontispicio de lo que es también la preparación de todas sus intervenciones en esta materia y le recuerdo que la constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales la constitución española usted niega

y no se me ocurre otra mejor definición que la concreción de la nacionalidad sea una nación se constituyó en comunidad autónoma usted niega la realidad del pueblo vasco recogida en el estatuto señor maneiro

podemos hablar de territorios forales se puede hablar de comunidad foral no se puede hablar de nación foral

propio único y singular de los derechos históricos nuestras libertades originales preservadas mediante pacto estatuto de autonomía ley orgánica

mire ante su negación permanente le recuerdo los principios del espíritu estatutario de mil novecientos setenta y nueve

bilateralidad pacto y garantías a pesar de que el estatuto es una ley orgánica a pesar de que la constitución reconoce las nacionalidades y contempla expresamente la actualización del régimen foral basado en los derechos históricos y esto es la constitución española también señor maneiro

y su cumplimiento con garantías no hablamos por tanto de imposibilidad legal sino de falta de voluntad política mantengo que tenemos la oportunidad ahora de identificar un espacio de encuentro para avanzar en el autogobierno alcanzar el reconocimiento como nación y seguir construyendo euskadi en una europa más fuerte
y abierta reivindico en esta cámara por lo tanto una mirada positiva y constructiva seamos propositivos señor maneiro eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias señor lehendakari le interpelo

para que todos los ayuntamientos vascos donde hubo víctimas de eta homenajeen a estas víctimas de eta como se merecen que es una reivindicación que llevamos defendiendo

y ciertamente el gobierno vasco no ha hecho todo lo que estaba en su mano para propiciar esos actos de homenaje en cada uno de los municipios donde hubo

de la banda terrorista eta le pregunto por lo tanto por las acciones que piensa adoptar para que todos los ayuntamientos vascos donde hubo víctimas de eta homenajeen como se merecen a esas víctimas del terrorismo lo cierto es que hace algunas semanas usted organizó una reunión

del partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y bildu para impulsar la realización de homenajes a víctimas de eta y a supuestas víctimas de abusos policiales

dos cosas por cierto las cuales confirman que usted impulsa

la teoría de conflicto político por un lado llama poderosamente la atención que a esa reunión usted no invitara formal mente al partido popular

me dice la señora quiroga que no cite al partido popular pero hay que

uno de los partidos políticos el principal partido político que más ha sufrido

me llama la atención y creo que no solamente lo he dicho yo otras personas lo han venido diciendo

en esto no importan las siglas en esto no importa a qué partido político representemos se me hace raro es extraño que a una reunión se supone se van a poner las bases para poder homenajear a todas las víctimas de eta en aquellos municipios donde hubo víctimas de eta no se invite al partido popular ha habido quien ha escrito que también había que haber invitado a upyd y algún otro partido político en fin esto en concreto me importa menos pero una fuerza política como el partido popular parece razonable que pudiera estar en esa reunión llama la atención que invite usted a bildu y no al partido popular para homenajear a víctimas de eta es ciertamente extraño

es que el partido popular no gobierna ningún municipio donde hubo víctimas de eta no importa no importa es el gesto son las formas y el gesto y las formas importan mucho en una democracia por eso como consecuencia de estas actuaciones y estas formas de proceder hay quien denuncia que ustedes están impulsando por la vía de los hechos la teoría del conflicto político y por eso hay muchas víctimas del terrorismo

con usted y con su política porque el señor jonan fernández

lo es directamente usted como máximo responsable de estos hechos y otra cosa que llama la atención es su pretensión de mezclar

con otras y esto no solamente lo ha criticado upyd en las últimas semanas lo ha criticado también el partido popular lo ha criticado también el partido socialista de euskadi

a unas víctimas con otras supuestas víctimas u otras víctimas en algunos casos pues ciertamente también fomenta la teoría del conflicto político por qué

mezclar a unas víctimas con otras cuando independientemente del sufrimiento de cada una de ellas reflejan realidades diferentes y la pretensión de mezclarlas es una muy mala idea que ya digo fomenta la teoría del conflicto político que algunos quieren

el gobierno vasco en lugar de organizar homenajes en todos los lugares donde hubo víctimas de eta modificó el criterio anterior y el mapa de la memoria para confundirlo todo para contentar a batasuna y ya digo defender del conflicto político por lo tanto tenemos esa reunión tenemos esa pretensión de mezclar a unas víctimas con otras y tenemos el listado de homenajeables que ustedes han elaborado en estas últimas semanas y esto es también

presenta a veintiuno etarras como víctimas porque incluye algunos casos de suicidios y media docena de fallecidos por afecciones cardiacas de cáncer

los autores del informe han hecho caso omiso a la existencia de resoluciones judiciales que han eximido de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y usted esto no lo tienen en cuenta y esto es un escándalo esto es un insulto no solo se ignora sino que voluntariamente se ocultan fallos de la justicia española

ya digo que es un escándalo además de a veintiuno etarras su gobierno propone tratar como víctimas

y la policía pero es que se incluyen nombres aunque los casos hayan sido investigados y archivados por la justicia incluso por tribunales franceses

en un hospital se incluyen a personas que fallecieron por causas naturales y por enfermedades varias se pone en duda determinadas actuaciones de la ertzaintza que atutxa en su momento o ibarretxe defendieron ante

se alude a fallecimientos que se registraron dos años y medio después de una actuación policial y otros señor lehendakari pero quién ha hecho este informe

quién ha hecho este informe esto es una barbaridad lo que aquí se propone son errores es alguien que no sabe hacer las cosas bien o hay una voluntad política de confundirlo todo estos son hechos

como víctimas a quienes no han sido víctimas y no hay sentencias no hay caso además de la pretensión ya digo de mezclarlo todo encima en ese listado incluye a personas que no pueden ser consideradas víctimas en ningún caso quién ha hecho este informe

qué van a hacer con este informe quién es el responsable de todo esto la dimisión de jonan fernández en fin ya la hemos pedido en varias ocasiones ahora el responsable es usted quién controla a este señor

quién le prepara los informes conocimos también el informe que preparó en relación a los

por eta pendientes de resolución otro desastroso informe

y se introducían datos erróneos pero esto qué es qué es incapacidad es voluntad política para confundirlo todo para mezclarlo todo

cuál es la pretensión de este gobierno no da para más señor lehendakari espero que todo esto nos lo pueda explicar gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro he escuchado con interés y atención su intervención

o de la secretaría general de paz y convivencia permítame

se configura y se ejecuta esta iniciativa relativa a los retratos municipales sobre las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco de manera que pueda transmitir a la cámara y también a usted el hecho de que no se ha trabajado en torno a una barbaridad

una vergüenza como la ha calificado usted sino una iniciativa que puede tener sus detractores puede tenerlos pero que está

inspirada en los principios que fundamentan el plan de paz y convivencia y que persigue objetivos creemos que ampliamente compartidos por la sociedad vasca y por el conjunto de las fuerzas políticas sin perjuicio

como en todas las iniciativas que son fruto de la

mire la acción cuarta de la iniciativa número cuatro del plan de paz y convivencia prevé de manera literal promover el desarrollo de un mapa de la memoria esta actuación está directamente relacionada con el impulso de una política memorial desde el ámbito municipal una línea de actuación que no es novedosa de esta legislatura que ya se puso en marcha la anterior legislatura a iniciativa precisamente del parlamento vasco aunque con un desarrollo limitado el plan de paz y convivencia por tanto recoge el objetivo de reimpulsar el mapa de la memoria una iniciativa que consiste en promover de acuerdo con los ayuntamientos una política memorial que recuerde la injusticia del terrorismo y de la violencia en este sentido el veintinueve de mayo del año dos mil catorce

presentó un documento que posteriormente remitió a todos los ayuntamientos a todos que incluía recomendaciones incluía sugerencias

que pudieran contribuir a la realización de estos actos de la memoria en el ámbito local este documento sirvió después de base para establecer un diálogo cooperativo tanto con los ayuntamientos como también con las fuerzas políticas con todas las fuerzas políticas de cara

memoriales que tenían vocación de implantación en el ámbito municipal el diecisiete de diciembre del año dos mil catorce

el secretario general de paz y convivencia compareció en esta cámara concretamente ante la comisión de derechos humanos para ofrecer un balance

de lo que había hecho el gobierno vasco para promover actos de política memorial desde los ayuntamientos en conjunto esa información que transmitía el secretario general de paz y convivencia en aquella comparecencia habían sido veintidós los municipios que a lo largo de ese año del año dos mil catorce

el día de la memoria ello representaba estos municipios

del conjunto de la población vasca en la gran mayoría de los casos en la gran mayoría de los casos los actos se desarrollaron con arreglo a un programa que había sido fruto del consenso municipal transversal en aquella comparecencia esto está extraído del diario de sesiones el

decía literalmente esto que le voy a leer la misma dificultad con que nos encontramos

a la hora de consensuar cuestiones referidas a la memoria se encuentra también en el ámbito municipal la misma dificultad nuestra falta de consenso aquí en el parlamento precede a aquella el logro de consensos en materia de memoria en el ámbito parlamentario vasco se traduciría en una multiplicación de actuaciones memoriales en el ámbito local en todo caso los ayuntamientos están ya haciendo un recorrido y en muchos casos han alcanzado ya consensos importantes

comparecencia poniendo de manifiesto que las dificultades que existen para alcanzar consensos en esta materia aquí mismo en el parlamento y en los órganos creados por el mismo

se reflejaban evidente e inevitablemente también en el ámbito municipal pues bien la experiencia de diálogo con los ayuntamientos nos permitió detectar algunas lagunas

que al pretender promover actuaciones memoriales se encontraban con una información fragmentaria e insuficiente sobre las víctimas que la violencia

durante los cincuenta años en sus respectivos términos municipales y de este

al que me refiero el proyecto retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco un trabajo que es sumamente laborioso pero que ha permitido que ciento treinta

no declarativo informativo pero sí específico sobre el municipio que recoge esta información esta documentación la que se ha remitido a los ayuntamientos se ha elaborado revisando prácticamente

en el ámbito de las víctimas los elaborados por el ministerio de interior los del gobierno de navarra los elaborados con anterioridad por el propio gobierno vasco las asociaciones de víctimas medios de comunicación y autores particulares

todos estos datos con rigor es una tarea compleja y delicada compleja porque existen diferencias sensibles entre unas bases de datos y otras

de asuntos que afectan al sufrimiento de personas concretas y de familias concretas

de todos modos el contraste realizado permite afirmar que esta información disponible por la secretaría general de paz y convivencia y que la secretaría ha puesto en manos de los ayuntamientos ofrece una imagen muy aproximada

objetiva de los hechos y nos enfrenta con crudeza desabridamente a nuestro pasado y en el marco específico de cada uno de los municipios que padecieron

un retrato municipal y humano de lo que no debe repetirse y así se deja claro a todos los efectos

ni olvidarse y el título del documento además incluye la palabra retrato porque un retrato

tiene cara tiene ojos y tiene expresión un retrato representa a una persona concreta con nombre apellidos amigos biografía personal sueños aspiraciones y proyectos

del sufrimiento de cada víctima injustamente asesinada porque estamos hablando de víctimas de vulneraciones del derecho a la vida una vez este trabajo quedó culminado

y en enero del año dos mil quince en aquel momento se entrega a quienes ocupaban las alcaldías en las tres capitales de los tres territorios históricos de la comunidad autónoma al señor carlos izaguirre juan carlos izaguirre en donostia al señor ibon areso en bilbao y al señor javier maroto en vitoria después

y en julio ya entregamos en mano el documento a los alcaldes de algunas de las localidades con mayor población en aquel momento ya anunciamos

con todos los alcaldes de municipios que cuenten con víctimas de la violencia con víctimas mortales causadas por el terrorismo o la violencia en su término municipal

el cuatro de septiembre celebramos este encuentro y entregamos a cada alcalde la documentación relativa a su municipio en aquel acto animamos a los alcaldes a desarrollar una política pública de memoria en el ámbito municipal buscando siempre

consenso posible y desde entonces mantenemos diálogos con alcaldes y ayuntamientos tratando de colaborar en el impulso de las actuaciones de política memorial en el ámbito municipal y en concreto

estos son los hechos concretos señor maneiro que reflejan una trayectoria indudable de compromiso con la memoria de las víctimas y también y esto es inevitable en este caso

de respeto a la autonomía municipal porque son ambos elementos que es preciso conciliar en una iniciativa de estas características que pretende arraigar en el ámbito municipal

la imposición es cosa de otro tiempo buscamos el diálogo con los ayuntamientos y animamos a que los ayuntamientos busquen el consenso político municipal diálogo
y cooperación este es nuestro camino eskerrik asko erkoreka jauna

no sabe no contesta sobre esta cuestión relevante que le afecta directamente a él en todo caso señor erkoreka sí efectivamente todo eso que usted

y no me ha respondido a nada a ninguna de las tres preguntas básicas que he realizado usted no ha respondido a ver si en el segundo turno usted responde y es capaz de explicar las razones que están detrás de esas tres preguntas que yo le hago la reunión

alcaldes donde hubo víctimas de eta

por qué no invitan al partido popular a esa reunión una segunda pregunta que he realizado antes y que no se me ha contestado por qué no

ponen en el lugar que se merecen a esos representantes políticos y a esos partidos políticos

los que más han sufrido la lacra del terrorismo durante los últimos años invitan a esa reunión a gente que no condena a eta como estos señores que tenemos aquí delante

al partido popular explicaciones por favor si quiere dejamos al margen los adjetivos calificativos pero sí que pido explicaciones para entender las razones por las cuales invitan a bildu que no condena a eta

y dejan fuera a un partido político democrático o a varios partidos políticos democráticos por qué insisten en la idea de mezclar a las víctimas de eta con víctimas de abusos policiales por qué para qué

que se nos explique con pelos y señales por qué se pretende hacer esto que se nos diga cuál es la razón por la cual el gobierno vasco decide vamos a mezclar a partir de ahora a las víctimas de eta con víctimas de abusos policiales de los aquí presentes el pp se ha mostrado

en contra de esa idea y upyd se ha mostrado en contra de esa idea parece ser que los señores que siguen sin condenar a eta comparten esta idea no es mejor que ustedes estén más cerca de esos partidos políticos democráticos que

que no son democráticos porque no condenan a eta pero en todo caso por qué esa pretensión de mezclar a unas víctimas con otras víctimas por qué

en nuestra opinión lo que se pretende es enredarlo todo confundirlo todo manipular la historia y defender la teoría del conflicto político esa es nuestra teoría otra cosa sino no se entiende y tercera pregunta viendo el listado he dado una serie de datos concretos

sobre personas específicas que se incluyen en ese listado y que está perfectamente demostrado que no son víctimas porque hay resoluciones judiciales

por qué se incluyen a etarras pero por qué se incluye también a personas que fallecieron incluso por causas naturales incluso en el caso de personas que

afectan sentencias que absuelven tanto a la ertzaintza como a la policía nacional etcétera por qué son

específicas que el gobierno vasco tiene que responder por cierto no me hable de competencias municipales yo creo que este es un asunto que va mucho más allá

insisten en que este es un asunto municipal y que tienen que respetar las competencias municipales hombre esto va mucho más allá que

municipal estamos hablando de la memoria de decenas centenares de víctimas de eta estamos hablando de contar la verdad de los hechos ocurridos estamos hablando de deslegitimar a eta estamos hablando de homenajear a las víctimas de eta

no se puede circunscribir en el ámbito municipal en todo caso son cuatro preguntas específicas que yo le he hecho lo que usted me ha contado todo eso ya lo sé cuatro preguntas

porque sabe los errores que se han cometido voluntariamente con este informe por lo menos responda usted a las preguntas que yo le he realizado

señor maneiro asumo que soy poca cosa para responderle a usted entiendo que

pero desde mi humildad le debo recordar que esta misma cuestión fue suscitada por usted en el debate

y que el lehendakari le dio cumplida respuesta a todas sus inquietudes su problema es que nunca se da por respondido porque siempre insiste y vuelve repite y reitera los mismos ítems de una manera insistente con toda la legitimidad lo puede hacer

entonces como lo hace sistemáticamente pues nunca se da por respondido por nadie

pero bueno seguro que la próxima vez volverá a plantear estas mismas preguntas

esta iniciativa creo que he dejado constancia de ello al principio de mi intervención no es la única de entre las que contempla la secretaría general de paz y convivencia y en concreto

a propósito del reconocimiento de las víctimas es solamente una una que pretende

en los actos memoriales es una más una más que se suma a las anteriores si fuera la única

le atribuye podrían adquirir especial relevancia pero es que no es la única

que se hacen con el máximo consenso posible con las formaciones políticas con las asociaciones de víctimas y por tanto no puede generalizar los

para qué tanta parafernalia vacía en los primeros días de septiembre con los alcaldes de los municipios que han experimentado casos de terrorismo en su ámbito territorial

intentar impulsar políticas memoriales con todos los municipios de euskadi convocando a sus alcaldes

de diferentes formaciones políticas para que contribuyan con el gobierno en la política de reconocimiento de las víctimas desde la plataforma municipal le parece de verdad una parafernalia irrelevante

hombre está bien que descalifique las iniciativas del gobierno para eso está en la oposición pero no

en este compromiso no me parece irrelevante ni secundario me parece una cosa muy importante

no es culpa del gobierno el que haya formaciones políticas que no adquieren alcaldías en municipios que se encuentran en esta situación pero la iniciativa no era hablar primero de partidos políticos era hablar con los alcaldes con los municipios era implicar a los alcaldes ahora bien

se habló con las formaciones políticas y el lehendakari personalmente envió cartas a los presidentes de todos los partidos políticos para

con todos habló con todos y explicó las razones los motivos de la iniciativa con todos pero no era una iniciativa que pretendía unir a partidos políticos sino a municipios a través de sus alcaldes a municipios con el máximo de pluralidad posible y el mensaje que se les trasmite es además que promuevan actos de reconocimiento de las víctimas desde el consenso

desde la búsqueda de iniciativas compartidas por la representación municipal usted me dice no convocó al pp

no se convocó a ninguna formación política se informó a todas las formaciones políticas pero la iniciativa en esta

se articulaba a través de los municipios a usted le parece irrelevante le parece una convocatoria vacua a mí no me parece tan vacua

mezclamos a unas víctimas con otras no no en absoluto mira la propia dinámica de las relaciones con las víctimas y sus asociaciones

conduce a hacer un planteamiento como el que se ha hecho el de reconocimiento de las víctimas de vulneraciones del derecho a la vida la propia dinámica de relación con las víctimas no es una iniciativa del gobierno o una idea aislada del gobierno no

a un planteamiento de ese tipo no se mezcla unas con las otras porque se identifica perfectamente cuál es la situación de cada una de las que aparecen en los retratos municipales

luego me hablaba un montón de casos que me dice que no son casos de víctimas mire se lo he dicho en la primera intervención

a los ayuntamientos no es declarativa es puramente informativa y se dice expresamente en muchos casos que hay asuntos todavía por investigar se dice expresamente

usted en el pleno de política general del pasado jueves puso de manifiesto que la transparencia y el buen gobierno eran imprescindibles para el buen funcionamiento de la administración y para generar confianza en la ciudadanía y nosotros no podemos estar más de acuerdo con ello y nuestra mano tendida para conseguir este objetivo

que esa apuesta por la transparencia y el buen gobierno no se pueden quedar en palabras huecas y que debe ir acompañada de hechos y esos hechos a veces

dicen todo lo contrario así por parte de este grupo se presentó en marzo del año pasado una proposición de modificación de la ley siete barra ochenta y uno de buen gobierno para garantizar la transparencia

y la verdad es que la disposición estaría dispuesta para ser debatida y aprobada pero desde junio del año pasado es decir ha pasado ya más de un año sigue sin convocar la comisión de instituciones presidida por el partido nacionalista vasco supongo que esta sería la paralización a la que se refería el señor egibar la semana pasada

de la preocupación por la transparencia es el funcionamiento de su comisión ética comisión que dijo que había emitido treinta y cuatro resoluciones permítame que sea recelosa con esa comisión que es una especie de comisión juan palomo

la mayoría de la comisión corresponde al gobierno y esto le resta credibilidad como le resta credibilidad a algunas de las resoluciones que ha emitido algunos casos ya los hemos citado aquí y tendremos ocasión de hablar pormenorizadamente de ellos en próximos debates pero hay uno más

ese órgano entre cuyas competencias está la emisión de documentos en los que se comunican a los

aprobó a propuesta de su presidenta la consejera el nombramiento de doña eva ferreira garcía como directora de la agencia esta persona ha sido citada como imputada en un juzgado de instrucción de vitoria

el nombramiento queda sin efecto pero el catorce de julio esa comisión ética del gobierno aprueba a que se haga efectiva el nombramiento y dice que la señora ferreira puede continuar en su cargo

la verdad es que choca bastante señor lehendakari que se ponga

de quien está encargada de elaborar documentos públicos a quien precisamente

público es como si se pone de cajero de kutxabank a alguien que está imputado

la frivolidad pero desde luego suena muy raro usted también

y que remitirá antes de finalizar el año el proyecto de ley de transparencia y buen gobierno desde el año dos mil trece

que se aprobó la normal estatal ha habido tiempo pero en fin nunca es tarde si la dicha es buena

es cuál va a ser el contenido de esa ley si de verdad tiene el objetivo de además de garantizar el escrutinio por parte de los ciudadanos de la toma de decisiones de la utilización del dinero público

y va a procurar fórmulas para evitar una cuestión que les guste existe en euskadi señor lehendakari y hablamos del clientelismo político y es que en euskadi en los ayuntamientos en las diputaciones en el gobierno vasco en las sociedades públicas claros ejemplos de clientelismo político en muchas instituciones vascas muchos empresarios no tienen oportunidades porque parece existir trato de favor en las adjudicaciones públicas siempre a determinadas empresas en manos de personas vinculadas siempre a un mismo partido al suyo señor lehendakari

porque manifiestan que ya están dados de antemano y siempre a los mismos señor lehendakari será casualidad que siempre las mismas empresas vinculadas siempre a cargos ex cargos familiares y afines de un mismo partido

será casualidad digo que si uno hace un seguimiento de las contrataciones realizadas por distintas instituciones también del gobierno vasco por ejemplo con constructoras aparecen casi siempre las mismas y que si uno va a comprobar quién forma parte de esas constructoras siempre aparecen cargos afiliados o afines al pnv será casualidad que si uno

de servicios culturales o sociales aparecen siempre sociedades en cuyos cargos directivos están cargos públicos del partido nacionalista vasco que si uno comprueba a quién se han adjudicado empresas que a renglón seguido entrar en concurso de acreedores

será casualidad señor lehendakari que si uno va a etb ve que las productoras con las que mayoritariamente se contratan han estado integradas por cargos del partido nacionalista vasco o por personas

a renglón seguido la dirección de la propia televisión pública vasca

y pertenecía hasta poco antes de ser nombrado al actual director

de la programación del ente y por tanto de la contratación con productoras y hoy aparece en la prensa

un caso que supone un salto importante tanto por el montante de lo adjudicado como por el número de empresas

constituye un auténtico lobby hijos sobrinos

de quien fuera presidente de este parlamento y consejero del gobierno vasco alaike ingeplan kies iaz ekin y puedo seguir

muchas empresas y todas siempre relacionadas los mismos están siempre en muchas de esas empresas existe todo un glosario de sociedades que resultan adjudicatarias de los contratos en los que la

al partido nacionalista vasco y la afiliación con cargos del partido nacionalista vasco es la nota característica y yo le pregunto señor lehendakari a usted le parece esto normal le parece esto aceptable no creen

es verdad que en euskadi también ha habido casos de corrupción y muchos muchos más ejemplos de clientelismo político porque algunos han hecho del clientelismo político un auténtico modus vivendi y las puertas giratorias entre lo público y lo privado en ocasiones giran tanto que llegan a marear

enfrentarse a ello está usted dispuesto a hacerlo señor lehendakari está dispuesto a enfrentarse a ello porque para ello para enfrentarse a esto para evitar el clientelismo político

no puede ser que tengamos que aceptar como algo absolutamente normal que los cargos públicos del partido que gobierna en la mayor parte de las instituciones de euskadi es decir del partido nacionalista vasco

no puede ser que se asuma con naturalidad no puede ser que parezca que forma parte del paisaje de este país

tenemos que cambiar la filosofía política no puede ser que parezca que ser del pnv es el salvoconducto para ser adjudicatario de licitaciones públicas de ayudas y de subvenciones de la administración y también es necesario que se pongan en marcha las medidas pertinentes para que esto no suceda

nuestra interpelación sería una buena oportunidad para ello pero está dispuesto a hacerlo su gobierno señor lehendakari está usted dispuesto a hacerlo

sería realizar de forma detallada un histórico de todas las licitaciones que tienen las empresas y cuando aparece una empresa que se vea todos los que han tenido y seguramente y quien forma parte de esos órganos sociales y de la dirección de esas empresas

en un pantallazo saltarían las luces rojas y se verían que las coincidencias van mucho más allá de la casualidad señor lehendakari

una oportunidad desde luego para garantizar que los ciudadanos conozcan cómo funcionan de verdad nuestras instituciones y a dónde va el dinero público una oportunidad para que la comisión ética

sirva de verdad para garantizar que aquellos que ocupen cargos están libres de toda sospecha de comportamientos poco éticos una

esa filosofía política a la que le hacía referencia para que el clientelismo político no se admita como algo normal para garantizar la transparencia y la igualdad de trato en las contrataciones para alejarnos de una cuestión que desde luego merece que nos alejemos de ella señor lehendakari por eso le interpelo va a aprovechar la futura ley de transparencia y buen gobierno para ello o no está interesado en absoluto en hacerlo
escucharemos atentamente su respuesta eskerrik asko

señora llanos hay casos elocuentes de iniciativas parlamentarias de fórmula interpelación que se formulan por escrito en unos términos y después

usted da una orientación al texto escrito que registró en esta cámara para

no ha hecho una intervención radicalmente desconectada con aquella inicial pero es cierto que ha introducido

ocupado el núcleo fundamental el ochenta por ciento de su intervención que solo tangencialmente tienen que ver con la preocupación honesta

de control de la contratación pública yo le voy a contestar a su interpelación escrita fin parece que suscita su interés pero no puedo dejar de hacer dos observaciones dos precisiones muy puntuales a incorrecciones objetivas que ha formulado usted desde la tribuna primero hablaba usted de la comisión ética y la identificaba con esa frase de palomo yo me lo guiso yo me lo como

esa es una comisión en la que la mayoría es del gobierno perdone si se lee la ley de procedimiento administrativo y se lee

que de las cinco personas que integran la comisión una es la secretaria con voz pero sin voto

y si se ha leído las resoluciones que ya veo que no habrá podido comprobar que en todos los casos hasta la fecha

por unanimidad es decir que no se somete a votación y la mayoría del gobierno se impone frente a los externos no no los que marcan la pauta son los expertos externos si usted quiere descalificarlos empiece por descalificarlos yo creo que son gente de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos

si usted quiere descalificarlos descalifíquelos pero la composición es paritaria y las decisiones todas son por unanimidad todas por unanimidad no hay votaciones no hay imposición del gobierno de su criterio segundo usted me hablaba del caso unibasq bueno

siguiendo un tono que no es privativo de la misma cuando dice por ejemplo que un alto cargo

a partir del momento en que la eventual imputación de la que pueda ser objeto pasa

pero fíjese el gobierno popular en madrid las cortes generales acaban de aprobar una ley hace unos meses

que el alto cargo sigue siendo alto cargo hasta la sentencia condenatoria es decir que el criterio que ustedes el partido popular acaban de aprobar en cortes generales en una ley sobre altos cargos

y la sentencia condenatoria hay diferencia esto es lo que hay en su interpelación el punto central es la idea del clientelismo político

que se refiere a ese fenómeno pero es un concepto muy amplio muy heterogéneo y además que se puede analizar

el antropológico el sociológico el politológico el histórico el jurídico a usted a tenor no de su intervención de hoy

parece que lo que le interesa es la cuestión jurídica la dimensión estrictamente jurídica quiere saber cuáles son las técnicas los instrumentos jurídicos que pueden incorporarse a la ley para limitar para impedir para combatir digamos el clientelismo político y particularmente le interesan las medidas que pueden plantearse en el ordenamiento jurídico para limitar para combatir el clientelismo político en el ámbito de la contratación administrativa porque el clientelismo político se da y se ha dado en otros muchos ámbitos también de la actuación pública

en galicia en las infraestructuras en las subvenciones en muchos ámbitos más aún le importa y le preocupa es el estudio de las medidas jurídicas que pueden adoptarse para combatir el clientelismo político concretamente en la fase de adjudicación de la contratación pública

qué pasa con la ley de transparencia que el gobierno prometió y el lehendakari anunció que próximamente estaría en la cámara en relación con este asunto le puedo hacer dos observaciones primero en efecto el gobierno vasco está tramitando este anteproyecto de ley

avanzado estado de tramitación en el marco del procedimiento establecido para la elaboración de

un proyecto de ley y por tanto estamos haciendo en el texto los últimos toques

en pocas semanas no se lo puedo precisar cuándo pero próximamente estamos trabajando en ello segundo

no creo que la ley de transparencia sea el instrumento idóneo el adecuado para abordar la regulación material

político en la contratación administrativa que es la que parece que le interesa a usted para eso hay otros instrumentos legislativos mucho más adecuados la ley de transparencia sí puede contribuir a crear el humus el hábitat en el que el clientelismo político tenga dificultades para emerger y para desarrollarse pero no va a impedir no va prohibir por sí mismo la existencia decisiones y de actuaciones que puedan ser calificadas o incursas en el ámbito del clientelismo político para eso hay otras normas está la normativa reguladora de la contratación administrativa la ley de

la vigente se aprobó en el año dos mil once y está toda la normativa que regula los conflictos de intereses

llamadas básicamente a regular esas cuestiones

el gobierno central está planteando la reforma de la ley del contrato del sector público hay un anteproyecto que está dando vueltas por el ministerio

porque hay tres directivas por transponer antes de mediados del año que viene y por tanto no se va a poder demorar excesivamente

los casos de corrupción y los conflictos de intereses en la contratación administrativa pero yo creo que la legislación en materia de contratos públicos es bastante exigente en este momento en lo que se refiere a impedir las cosas que dice usted esa contratación con los familiares con los afines con los amigos con las gentes con parentesco es muy contundente a ese respecto y la normativa

el problema es que los grandes casos de corrupción en españa no se dan por contratar con los parientes y amigos no se dan

si repasamos los casos de bárcenas de correa la púnica matas rato en todos estos casos no hay ninguna contratación con parientes hay testaferros pero no parientes que es lo que parece que le preocupa a usted bueno en cualquier caso dónde en qué estado se encuentra

de transparencia mire el proyecto de ley de transparencia de cara a lo que a usted parece que le interesa la transparencia

que desarrolla perdón el artículo veintiocho

un texto del anteproyecto que estamos trabajando que intenta desarrollar el artículo

aprobaron las cortes generales en diciembre del año dos mil trece la ley de transparencia de acceso a la información y buen gobierno que seguro que la conoce bien ese artículo recoge

en el que se recoge toda la información que las administraciones públicas tienen que hacer pública en relación con la contratación administrativa

pues esas previsiones del artículo ocho están amplísimamente desarrolladas en el anteproyecto de ley que estamos elaborando nosotros en el artículo veintiocho en concreto

contra la ley de administración el proyecto de ley de administración pública aquella que el gobierno retiró

pero este nuevo texto se ha hecho sobre la base de incorporar al texto inicial muchas de las enmiendas que presentaron ustedes en este capítulo concretamente en el capítulo de información económica que tiene que hacerse pública

quince en concreto del grupo parlamentario popular y en concreto las que se refieren a esto que comenta usted la información relativa a la contratación

el partido popular están incorporadas al texto el resultado cuál queremos que sea

el umbral de la publicidad activa en el ámbito de la contratación sea superior al establecido con carácter básico por la normativa del estado y superior al conjunto de las comunidades autónomas y por supuesto superior al fijado por las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular como castilla león y valencia que aprobaron leyes

gracias señora presidenta bien

preparando la interpelación me lo esperaba desde luego resulta decepcionante resulta decepcionante que en un tema importante como es este un tema en el que las instituciones queremos darle tanta importancia el máximo responsable del gobierno vasco el señor lehendakari

y usted señor erkoreka le reconozco su habilidad en dos cosas una en que me imagino

y dos en el ejercicio de escapismo que ha hecho que de verdad

porque es digno de verdad de ver el ejercicio de escapismo que ha hecho dice que usted me puede mandar el anteproyecto de la ley de transparencia mire si hubieran aprobado ya la ley que nosotros presentamos

sino que me lo hubiera tenido que mandar porque era obligatorio pero en fin al margen de eso

mire la comisión ética se lo sigo diciendo es un juan palomo yo me lo guiso yo me lo como es así hay paridad pero tiene voto de calidad el presidente que se toman por unanimidad de acuerdo y yo no pongo en duda

y es ético que alguien que está imputado por falsedad documental esté al frente de un organismo que se encarga de emitir documentos públicos

una visión de las cosas diferentes y usted le decía que ha hecho un ejercicio de escapismo porque no se ha referido a ninguno de los casos que yo le he dicho

ayudas o subvenciones a familiares amigos primos hermanos no porque eso está prohibido por la ley evidentemente sino que se le dan a empresas que están formadas

y puedo seguir con el parentesco de cargos del partido nacionalista vasco y que cargos

se van de una institución montan una empresa y luego esa empresa es siempre adjudicataria de contratos de otras instituciones gobernadas por el partido nacionalista vasco

claro que el señor atutxa no dio cuando era consejero o cuando era presidente de este parlamento contratos

y demás familia pero porque eso lo tenía prohibido por la ley pero ahora hoy ha aparecido sesenta y ocho millónes si no hay más que hacer el seguimiento que se pueden hacer cosas claro si uno pudiera en un pantallazo

de la contratación de cualquier administración y viera quiénes son los adjudicatarios quiénes componen los consejos de administración de esas empresas adjudicatarias

y cuántos contratos se le han concedido de cuántas instituciones saltarían las luces rojas porque son siempre

compuestos siempre por los mismos y por supuesto siempre vinculados al partido nacionalista vasco y yo lo que le he preguntado que no me ha contestado usted y se lo preguntaba al lehendakari es si están

si les parece normal porque claro para intentar acabar con algo lo primero que hay que reconocer es que no es normal a usted le parece normal

o a solicitar subvenciones o ayudas porque digan están dados siempre a los mismos claro

qué van a hacer porque hay medios para hacerlo primero hace falta voluntad lo que pasa es que ustedes aquí quieren reflejar esa arcadia feliz

de que las cosas suceden fuera de euskadi nunca dentro de euskadi y que aquí se habla de lo de fuera

jamás hacen referencia a los casos propios eso está proscrito y de mí

ni los demás pueden hablar ni los demás pueden hablar porque los medios de comunicación hay determinadas cuestiones como por ejemplo la rueda de prensa que dimos nosotros ayer que no la sacan por qué porque no porque ustedes son intocables y porque los

se lleven los contratos las ayudas y las subvenciones de las administraciones públicas eso
ustedes lo consideran normal pues no lo es hagan algo para evitarlo eskerrik asko llanos andrea

diciendo que iba a responder a lo que usted había consignado en su escrito aquí está lo reproducimos quiere que lo lea aquí por la tribuna qué es lo que usted plantea aquí no no

cuestiones claro tangencialmente usted lo que preguntaba aquí es cuáles son los propósitos de su gobierno

en relación con el proyecto de ley de transparencia y la posible inclusión de preceptos que eviten el clientelismo político y cuál era la estrella de su intervención una

sobre la base de la rueda de prensa que hicieron ustedes ayer hombre mire si

la actuación contractual de la administración pública es bastante contundente a efectos de establecer las prohibiciones para contratar y en concreto por lo que se refiere

le preocupaba a usted lo único no la transparencia ni la actuación regular de las administraciones públicas

eso está terminantemente prohibido por la ley terminantemente pero por la ley del estado y por la ley aprobada el año pasado por esta cámara la uno barra dos mil catorce del veintiséis de junio la prohibió terminantemente por tanto si ustedes tienen claramente

no hagan ruedas de prensa por favor están tardando en ir al juzgado

fíjense lo que se ha publicado hoy y lo que se ha publicado hoy era el fruto de lo que dijeron ustedes ayer en una rueda de prensa hombre por favor

reproches fundados en la ley vayan directamente a la fiscalía o directamente

al juzgado pero no pierdan el tiempo en ruedas de prensa si es realmente tan grave

la iniciativa yo le he dado la información que usted pedía efectivamente sobre la transparencia y ya veo que le interesa un comino la transparencia y la publicación de la información

por parte de las administraciones públicas usted ha querido encubrir con ese interés aparentemente angelical otro tipo de intenciones que ha venido aquí a exponer yo le he dado la información y usted es que no se ha hecho eco de ninguno de los datos que le he dado que hay cuatro enmiendas planteadas por ustedes que han sido incorporadas al texto por no interesarse no se ha interesado de verdad ni por el texto

al mismo discurso inicial mire se lo he dicho las prohibiciones para contratar de la legislación vigente están clarísimamente recogidas las prohibiciones para mantener o para celebrar contratos por parte de empresas en las que tengan participación

a los mismos están clarísimamente recogidas en una ley aprobada por esta misma cámara hace poco más de un año eso está prohibido eso es ilegal y por tanto planteen a las instancias oportunas la ilegalidad que tengan que denunciar y por lo demás la ley de transparencia

estamos insisto trabajando en ello si es que algo le interesa estamos trabajando en ella en próximas semanas lo tendrán aquí insisto si usted tiene interés de verdad la próxima semana le invito a que pase por mi despacho o vengo yo mismo aquí y se la enseño

y con mucho gusto incorporaremos nuevas aportaciones que tengan que decir aquí tengo el artículo relativo a la publicación de los datos relativos a las contrataciones aquí se dice por encima de lo establecido en la normativa básica del estado de obligatoria publicación por parte del gobierno vasco en relación con la actividad contractual los contratos programados los pliegos de condiciones técnicas administrativas

recogidos de sus enmiendas entre otras que supongo que

quieran incorporar al debate público otros aspectos que solo tangencialmente tienen que ver con estos porque insisto

la ley de transparencia no es el instrumento jurídico más eficaz no es el decisivo para

el partido popular formuló en el pasado pleno de política general queremos trasladarla hoy aquí y queremos sobre todo saber su opinión ese es el motivo de esta interpelación en la que el partido popular trae esta propuesta

porque creemos que puede ser una iniciativa para asentar un entendimiento común en algo básico y por eso lehendakari le pido que valore esta iniciativa como un ejercicio de entendimiento y de posibilismo en realidad lehendakari tengo que decirle que esta interpelación

un planteamiento una búsqueda de entendimiento entre diferentes sobre todo con aquellos

con los que más distanciados estamos pero cuyo concurso sabemos somos conscientes y reconocemos que es necesario para enfocar el presente y el futuro de euskadi tras el cese de la violencia de eta por el único camino posible

acuerdo común posible entre las distintas sensibilidades aquí representadas distintas es verdad pero que en un futuro de convivencia para los vascos

de que la violencia estuvo mal está mal y siempre estará mal o lo que es lo mismo la deslegitimación de la violencia de hecho esta misma cámara

y ayer mismo se pronunciaron unas palabras que para nosotros tienen una importancia y es que por parte de la izquierda abertzale se dijo que aquellos que utilicen la violencia les tendrán siempre en frente

que hasta ahora no lo han hecho yo creo que es algo que se puede tener en consideración porque si ahora se produjera algún hecho

condenaría esos hechos y por eso creo que es un buen propósito una posición justa imprescindible para construir nuestra sociedad

contra cualquier tentación nostálgica que pueda producirse teniendo como hemos tenido una historia en la que el uso de la violencia

a tantos inocentes a sus familias y a la misma sociedad vasca

ante la violencia les pido un paso más que reconozcan que esta tampoco debió producirse ese sería un gran paso y el conjunto de los vascos sabremos apreciar un pronunciamiento tan claro y tan necesario para poder abordar con total honestidad nuestro futuro en libertad partiendo precisamente

en el que se negó tal posibilidad a toda una sociedad y en particular a las inocentes víctimas del terrorismo esta es nuestra propuesta

un nuevo reinicio un nuevo reinicio en un nuevo tiempo un tiempo que no puede aunque algunos quisieran borrar el pasado la interpelación que proponemos lehendakari pasa por liderar

denominada de libertad y convivencia puesto que la actual ponencia

no aglutina acuerdos posibles le decía al principio que procurar olvidarse de los reproches y yo hago también ese ejercicio porque si nos atenemos a

abstraernos de todo eso porque esto iniciativa desde luego pretende

la ponencia actual y usted lo sabe no permite un punto de encuentro posible porque parte

ese suelo ético ese mínimo común denominador posible para de verdad sentarnos en una mesa que sirva

que sirva para hacer efectiva esa unión en lo indispensable que es lo que le pide la sociedad que es lo que nos pide la sociedad para sellar definitivamente la violencia de nuestras vidas las que hemos padecido los vascos y le tengo que decir también que nosotros

y creo que nuestra participación es indispensable como indispensable es el concurso de quienes no han tenido un posicionamiento contrario a la violencia de forma clara y sin justificaciones

imprescindible que quienes siempre hemos condenado todo tipo de violencia quienes la hemos padecido en nuestras propias carnes quienes la hemos sufrido y nunca recurrimos a ella

con quienes fueron cuando menos comprensivos un punto de encuentro cuando ese paso se haya dado sin ninguna contrapartida es cuando la política estará dando ejemplo y construyendo las bases para que esto no se vuelva a repetir pero eso sí sin ninguna contrapartida esto también

lehendakari quisiera que entendiera esta iniciativa como una propuesta abierta de nuestro grupo para canalizar la necesidad social de avanzar y convivencia y sabe que para ello debemos despejar dudas la duda que todos tenemos en la cabeza

que las palabras que aquí hemos escuchado y que ayer también repitieron

de rechazo a la banda terrorista que ha causado el noventa y dos por ciento de los actos de violencia en euskadi porque la concordia no es olvido

y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa hoy lehendakari porque es necesario construir ese futuro herritarren arteko itun bat ezinbestekoa da etorkizuna eraikitzeko

ituna un camino el de la convivencia y la libertad que hay que impulsar

nosotros estamos dispuestos enfrentarnos al pasado no es una opción reconocer qué hizo cada uno tampoco debería serlo el reconocimiento de la injusticia de la violencia el reconocimiento del daño causado

el de todos lo que hoy proponemos es superar el bloqueo de la ponencia actual lo que hoy proponemos es compartir un espacio entre todos

de los unos contra los otros lo que hoy proponemos es lo que consideramos el único camino posible para de verdad afrontar una convivencia en libertad en euskadi

bide bakarra y es por eso que le pregunto lehendakari cuál es su postura cuál es su opinión ante esta propuesta del partido popular para crear una nueva ponencia sobre

que parta de los principios éticos acuñados en la pasada legislatura y que son el único punto de partida imprescindible para iniciar un futuro

haciendo alusión también en varias ocasiones a pronunciamientos que han sido la semana pasada en esta misma tribuna y a los que

ha hecho referencia a huir de los reproches entiendo que también en los reproches

manifestaciones que de su grupo parlamentario he escuchado también en esta mañana pero en todo caso entiendo y saludo

el punto de encuentro al que usted quiere dirigir su intervención desde un reinicio en un nuevo tiempo que no olvide el pasado como usted lo ha dicho señora quiroga comienzo por reiterar lo que ya le dije la semana pasada usted puede presentar esta iniciativa ante la cámara y corresponde al conjunto de los grupos parlamentarios adoptar una decisión al respecto en todo caso

una asignatura pendiente y necesaria dicho lo cual créame si le digo que he analizado con sumo interés el escrito que ha presentado para justificar esta interpelación

y lo he hecho porque mi propósito como lehendakari es y sigue siendo ayudar a crear

la participación de todas las formaciones políticas en la ponencia de este parlamento en esa que está bloqueada partiendo de esa ponencia

y es el mínimo ético indispensable para construir el futuro es oponerse a cualquier historia justificadora de la violencia y efectivamente es esa frase literal que yo pronuncié en la reunión que mantuve con las víctimas

la mantengo y como usted propone no tengo problemas en que forme parte del mínimo ético de la ponencia

o de lo que resulte según su iniciativa de hecho uno de nuestros objetivos debe ser precisamente evitar cualquier historia justificadora de la violencia

que este es un compromiso común y compartido indispensable para asentar un trabajo útil para la sociedad y creo que corresponde también a los grupos en este parlamento tejer ese compromiso compartido porque lo que no cabe duda es que esa es la expectativa de la sociedad vasca

que la sociedad vasca espera de sus representantes de todas y de todos nosotros es capacidad para encauzar un doble objetivo que he formulado en esta cámara

y garantizar un principio renovador de la convivencia pero soy consciente de las dificultades y reconozco que existen pugnas partidistas ahora bien precisamente a nosotras y a nosotros nos corresponde favorecer los consensos políticos entre diferentes y yo estoy dispuesto a ello créame sinceramente

nos han dado una lección han sabido encontrarse dialogar superar el sufrimiento más íntimo y personal han querido realizar en la práctica

las víctimas de un signo o de otro signo y han adquirido un compromiso común

con toda humildad y honestidad y le sugiero que pudiéramos asumir este documento como punto de encuentro del que voy a citar solo los principios las convicciones

dice así creemos que los derechos humanos son un absoluto ético la violencia es inadmisible ha sido es y será un fracaso siempre

en ningún caso y bajo ningún concepto ni siquiera como respuesta a la mayor de las injusticias previamente sufrida es necesario conocer todo lo que ha sucedido

para aprender de ello y garantizar que no se repita jamás nuestra apuesta para el futuro es que la convivencia es posible esto es lo que dice una parte

de esta cámara a que manifiesten si comparten estos principios

estoy seguro de que ustedes sí si se comparte creo que hay un espacio común de trabajo en este parlamento que es la ponencia de paz y convivencia para avanzar sobre esa base firme si se comparten y asumen estos principios

aptitudes de exclusión ni de autoexclusión y me alegra escuchar de usted

saber que para sentarse en torno a una mesa no pidan que se levanten los que ya están sentados en ella habla usted de espacio compartido

en el que faltan ustedes falta el partido socialista falta upyd y creo que sobre la base de los principios anteriores y sobre la base del suelo ético comprometido creo que es posible retomar la acción reitero que soy consciente no obstante de las dificultades y por eso en el debate de política general quise anunciar

se presentará una vez pasada las elecciones porque también lo queremos trabajar con el próximo gobierno español y este acuerdo como no puede ser de otra forma volverá a tener el punto de partido el denominado suelo ético

suelo ético tal y como fue aprobado por este mismo parlamento tenemos por lo tanto muchas herramientas a nuestra disposición y vamos a seguir activándolas primando siempre el objetivo último

del gobierno que es el encuentro social usted me pregunta por los propósitos del lehendakari para retomar la participación de las formaciones políticas así lo dice textualmente

en una nueva ponencia y yo le reitero que no somos nosotros los que presentamos la iniciativa de una nueva ponencia son ustedes el gobierno se felicitaría si todos los grupos políticos comparten un espacio de diálogo en esta materia

compromiso de que el fin de eta no suponga pasar página sin clarificación reconocimiento ni crítica explicita sobre lo sucedido esto es lo que décimos compromiso de que la memoria y el honor de las víctimas no quede relegadas en una mirada al futuro que se olvida del pasado esto es lo que décimos compromiso de no reescribir

o las vulneraciones de derechos humanos así como a oponernos a ella y rechazar su uso

compromiso de que sin equiparaciones todas las víctimas también las producidas por los contra terrorismos ilícitos reciban el reconocimiento y la reparación que merecen también esto es lo que décimos compromiso de que el fin de la violencia no se transforme en revanchismo

sino en integración y vertebración social de la convivencia también esto es lo que décimos compromiso de que dentro del marco de posibilidades legales la normalización social aborde la cuestión de la política penitenciaria y también de la judicial

también esto es lo que décimos y compromiso de que el fin de la violencia

la normalización de la convivencia y haga posible el encuentro social tenga señora quiroga por seguro

el compromiso del gobierno vasco va a seguir siendo primar el consenso y la participación en cada actuación que pongamos en marcha que vamos a seguir actuando

y este puede ser el propósito compartido para retomar la participación de todas las formaciones políticas en esa ponencia y considero que el suelo ético

y los compromisos del plan de paz y convivencia son una base sólida para avanzar en la participación de las formaciones políticas que usted preconiza creo que sintonizamos

del grupo popular yo invito por lo tanto a todos los grupos parlamentarios a lo que pueda ser el debate legítimo de una ponencia nueva a crear sino sobre la ponencia existente basada en lo que es el suelo ético comprometido en la legislatura pasada y en esta legislatura actual más los pronunciamientos asumidos por quienes hasta ahora hemos dicho que

los asumamos para desbloquear la ponencia de paz y convivencia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta lehendakari entiendo que al final en los plenos de control

más o menos se prepara lo que va a decir y se ciñe

y yo creo que usted no he sido capaz de entender

es cambiar la estrategia porque la que usted está llevando a cabo no está funcionando

usted ha puesto aquí encima de la mesa muchos nombres muchas iniciativas yo las respeto por supuesto respeto a todas las víctimas del terrorismo

yo respeto todas esas iniciativas pero si usted hace un ejercicio de honestidad se estará dando cuenta

realmente solo están avanzando ustedes no se sabe a dónde pero no están consiguiendo que este parlamento que es

los ciudadanos avance ustedes se mueven ustedes hacen cosas

que es que uno parecería que lo que están buscando es que sigamos divididos porque el señor maneiro nos defiende aquí todos los días con lo que hicieron con los alcaldes fue feo

y uno parece que hay como una voluntad de que en lugar de buscar lugares de encuentro nos separemos cada vez más

y los dos polos opuestos que están ahí si esa estrategia la conocemos todos

y duele porque estamos hablando aquí de cosas muy serias y esa estrategia suya

que llevan a cabo desde la dirección la secretaría de derechos humanos eso no está contribuyendo a lo que la legislatura pasada entre todos fuimos capaces

y la voluntad era de sentar unas bases y conseguir

que sabíamos que en la siguiente legislatura en esta iba a venir al parlamento se uniera viniera

pero usted desde el minuto uno de esta legislatura está en otra estrategia

una estrategia que yo le respeto pero que cada vez queda más en evidencia

no construye la unión entre todos la convivencia

pero dígame en que ha avanzado esta sociedad en deslegitimación de la violencia

órgano de representación que es el parlamento vasco todavía no ha hecho una manifestación clara en ese sentido que eso haría avanzar

que lo resuelvan ellos en otro ámbito pero aquí estamos para representar a los ciudadanos y para construir una convivencia para el futuro que evidentemente tiene que ser desde un reconocimiento de lo que ha pasado aquí atrás lehendakari y yo entiendo que usted tenga una posición cómoda porque ha llegado aquí y ha dicho bueno si el parlamento quiere hacer esto pues que lo haga no yo que le voy a decir yo le digo que sigo en lo mío

es seguir solo porque usted sigue en una línea en la que no es capaz de aglutinar a todos aquellos que tenemos que estar ahí

por eso fracasa por eso esa ponencia que usted dice que está viva no está viva

que no es aceptable por eso creo que efectivamente ese debate se tiene que producir aquí en este parlamento efectivamente tenemos que ser capaces de avanzar entre todos y claro yo le apelaba a usted no solo como lehendakari sino también porque ustedes están sustentado en uno de los principales grupos de ese parlamento que es el grupo

y por eso quería saber su opinión y me siento defraudada sinceramente porque usted se ha quitado del medio el lehendakari se quita de medio de una iniciativa

podría tener la oportunidad de empezar de verdad

un nuevo tiempo pero con unas bases éticas
en las que nos pudiéramos reconocer todos gracias eskerrik asko quiroga anderea

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señora quiroga sinceramente creo que usted está absolutamente descolocada

qué tiene que ver esta segunda intervención suya con su primera intervención y con la iniciativa que ha planteado qué tiene que ver señora quiroga

y no como parlamentario de un grupo parlamentario que sustenta al gobierno y al lehendakari

para retomar la participación de las formaciones políticas que están representadas en esta cámara

ha hecho referencia usted en la primera intervención a abandonar el terreno de los reproches y viene en la segunda intervención y es

por eso le digo que está usted descolocada señora quiroga que

y está usted apelando a la creación una ponencia parlamentaria y lo vincula con el gobierno vasco que tiene su propio plan de paz y convivencia y que no estamos solos

porque creo sinceramente que siguen ustedes sin haberse leído las dieciocho iniciativas del plan de paz y convivencia y cuántos y quiénes son los agentes comprometidos en las dieciocho iniciativas del plan de paz y convivencia y el desarrollo de la misma me habla usted de la legislatura pasada

no estaba presente en la cámara y los acuerdos de todos los demás pero

y en su primera intervención habla de lo que es un propósito de acuerdo integrador entre todas las formaciones políticas dónde estamos cuál de las cartas tenemos que jugar se plantea usted también

que usted plantea en la interpelación que el parlamento nunca ha hecho una declaración que el lehendakari nunca ha hecho una declaración mire

y pone en cuestión que la base de la ponencia de paz y convivencia en esta legislatura no sea la misma

es la misma es lo que se denomina suelo ético señora quiroga y ustedes aprobaron que ustedes se sientan incómodos por sentarse con la izquierda abertzale

otra la base de la creación de la ponencia de paz y convivencia en esta legislatura

leída interpretada desde su mejor lado posible o desde su peor lado posible usted viene aquí y en la segunda intervención me reprocha con que

se ha ido por los cerros de úbeda y en todo caso el problema no es tanto que uno prepare la intervención en base a lo que es la interpelación

que supuestamente me escucha la respuesta a mi primera intervención no entiende lo que yo le estoy planteando mire yo quiero pensar que no ha hecho esta propuesta porque en el fondo cree que seguir instalada en el no y en una crítica no constructiva no conduce a ningún lado

quiero pensar que precisamente por esto ha hecho una propuesta que propone construir algo y no solo decir no quiero pensar que el problema no puede estar solo en la denominación

acuñados en la pasada legislatura conocidos como suelo ético

acuñados en la pasada legislatura conocidos como suelo ético y quiero pensar estoy seguro que el problema no puede estar en la contraposición

con el objetivo de sumar la enésima disputa partidaria a cuenta de la paz y la convivencia como me ha parecido en la segunda intervención de usted

cree que es necesario dar pasos y avanzar usted conoce mi compromiso y mi exigencia en esta materia lo conocen

y también lo conocen las víctimas quiero pensar que en el mismo momento en que termine este pleno va a dirigirse usted al resto de grupos parlamentarios para empezar a hablar sobre cómo retomar los trabajos que sobre la base del suelo ético nos permitan abordar de manera conjunta

egunen batean berdintasunaren kultura gure herrian guztiz txertatzea guztiz estamos comprometidos con la igualdad y seguiremos trabajando por un alarde que la garantice

garantiza que jaizkibel la única compañía que permite la participación igualitaria de las mujeres pueda desfilar nos gustaría como usted bien indica que estos plásticos o que los plásticos no se portaran significaría un paso ahora bien usted que también es defensora

ese derecho limita nuestra capacidad para prohibir la exhibición de plásticos negros y menos cualquier actuación para retirarlos en todo caso reitero mi criterio también de que me gustaría que esos plásticos no se portaran que significaría un gran paso eskerrik asko

irmo batean ez eman ezazu pausu bat aurrera urkullu jauna yo le invito a que imagine que es usted el padre de una chica joven que quiere desfilar conjuntamente con su cuadrilla

en el que quiere participar en igualdad de condiciones y se encuentra con que la calle recibe toda clase de agresiones

insultos vejaciones todo tipo de agresiones lo que no queremos para nosotras

el alarde pero los gobernantes en este caso las instituciones no solo usted la diputación foral de gipuzkoa y aquellos

forma parte de su partido tienen en sus manos la posibilidad de que eso no les suceda a otras familias

orgullosa de salir y disfrutar en igualdad de condiciones porque es indigno lo que sucede y de verdad hay mucho por hacer y si quieren

se lo repito nuevamente y usted se lo he dicho así usted también

ha de saber que desde el punto de vista jurídico el derecho

la prohibición de exhibición de plásticos negros y le he dicho también que qué más quisiera yo que desaparecieran los plásticos negros que creo que sería

sí quiero destacar que emakunde está proponiendo abrir un espacio de diálogo para recobrar la unión en torno al alarde y superar el enfrentamiento social de casi veinte años

tener acumulados y con la mirada atrás podemos decir que hemos avanzado con pequeños pasos y con pequeñas actitudes y hemos avanzado a un menor nivel de confrontación

seguiremos avanzando como sé también que la solución no vendrá de la imposición sino a través del diálogo y del consenso de todas las instituciones también de las instituciones locales que usted ha mencionado quiero recordar que son precisamente muchas las localidades que con el apoyo de la ciudadanía están dando pasos adaptando sus tradiciones

y esto no supone ir contra la tradición sino ofrecer los mismos derechos

a otros tiempos y enriquecer esa tradición yo subrayo lo que es el trabajo de emakunde como representante de lo que es

la que afecta a la administración vasca del gobierno vasco y emakunde va a seguir trabajando en la pedagogía y sensibilidad social a favor de la igualdad

egun on gracias señora presidente este verano nos ha dejado un balance desolador y muy preocupante en materia de violencia de género repasar los crímenes y las agresiones de estos últimos meses

los casos con resultados dramáticos y víctimas mortales han impactado con fuerza en la opinión pública vasca

y se pregunta cómo evitar este gravísimo problema social

con la esperanza de que nuevas políticas puedan arrojar mejores resultados

estas no han tenido los efectos óptimos deseados este verano por desgracia hemos tenido que manifestarnos para evidenciar nuestro rechazo a tales conductas y

barakaldo vitoria un año más las fiestas de diferentes localidades vascas

y atentan contra ellas con actitudes y comportamientos violentos y

con el convencimiento de que la preocupación es compartida por todos los grupos políticos y por la sociedad civil quisiera formularse señor lehendakari la siguiente pregunta se plantea su gobierno

señora ruiz la violencia contra las mujeres es efectivamente una preocupante realidad un atentado a los derechos humanos

aún existente en nuestra sociedad así lo manifesté ya que usted ha hecho referencia a los hechos

erradicar esta violencia es una prioridad constante del conjunto de las instituciones y así lo manifesté también en el debate de política general sustanciado en esta cámara la semana pasada y mostré la disposición del gobierno a consensuar e incrementar las medidas que sean necesarias

y reconocida la gravedad en todo caso quiero ofrecer un dato entre enero y agosto del año dos mil catorce el año pasado entre enero y agosto un total de dos mil ochocientos cincuenta y dos mujeres acudieron a la ertzaintza por violencia contra las mujeres dos mil ochocientos cincuenta y dos este año en el mismo periodo entre enero y agosto este año

con la comparativa no quiero minimizar la cuestión evidencian en todo caso que tenemos un grave problema para cuya erradicación tenemos que seguir trabajando porque un solo caso sería señal de preocupación

que regulan programas y servicios en este ámbito recogen todas las políticas vigentes todas ellas responden a líneas de trabajo que cuentan con un consenso internacional y se entiende que son las más adecuadas para avanzar en la erradicación de esta violencia ahora bien usted me pregunta por si me planteo o nos planteamos revisar

precisamente con este objetivo de revisar y mejorar sus políticas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

la respuesta escrita porque estaba a expensas de saber si

porque las políticas que se hacen y los planes que existen los conozco el tema está en que

acusando en época de fiestas vemos que se dan casos y de alguna manera corremos el riesgo también de interiorizarlo como si fuera algo inevitable el ejemplo igual no es el mejor pero como lo de la guerra de las banderas llega un momento en el que ya

pues con este tema me preocupa que pueda ocurrir lo mismo conozco el programa beldur barik

pero todo eso que era para anticiparnos a los casos de agresiones sexuales este año no han dado los resultados que se debiera

y hay algún dato es verdad que el tema de los datos todo depende hay maneras y maneras de compararnos

me preocupó este año cuando hablaban de un incremento del veinte por ciento de exámenes forenses por agresiones sexuales y no me parece el señor erkoreka lo calificó de significativo pero de puntual puntual

hasta que no tengamos datos de otros años eso no se puede afirmar así tan

el caso es que no nos podemos conformar con las inercias de políticas que se llevan haciendo desde hace tiempo y no acometer porque los resultados no son los deseados y sobre todo entre la gente adolescente por eso mi pregunta era y

confío en que nos den a conocer pronto sino haremos iniciativas

realmente esas políticas nuevas qué es lo que se va a revisar y qué es lo que se va a cambiar para que el año que viene no tengamos que volver a formular desde mi grupo político esta pregunta al lehendakari gracias

eskerrik asko legebiltzar buru andrea reconocida señora ruiz la gravedad de los hechos

reconocido además que estamos hablando de violencia de género de violencia doméstica

de una tipología o de tipologías también con sus matices en todo caso decir que los resultados no son los deseados

hacer una serie y una secuencia de lo que puedan ser los resultados pero a la mayor que es la gravedad de la cuestión y también apelando a lo que usted ha mencionado con el programa nahiko dirigido a las edades más tempranas

o el programa beldur barik dirigido a prevenir la violencia entre la juventud el plan de formación específico para el personal que operan los diversos programas y servicios existentes y todo esto

de determinados años pero insisto es grave la situación a nosotros nos preocupa pero no querríamos alarmar tampoco por datos puntuales de lo que es un verano sino también atendiendo a lo que son las comparativas y

la actitud de mejora de las medidas de sensibilización prevención y atención integral a las víctimas de violencia contra las mujeres es constante y creo

conocen al detalle estas medidas para su participación o por su participación en el consejo de emakunde como en la comisión de igualdad allí tendremos ocasión de revisar